ondoren bestetik el gobierno vasco y la diputación foral de bizkaia han realizado un enorme trabajo conjunto

que nos permita defender del mejor modo nuestros intereses y estos son los intereses de euskadi por tanto hemos trabajado conjuntamente hasta ahora y lo seguiremos haciendo también en adelante esta ha sido la base principal en la que hemos cimentado los principios fundamentales que deben regir el acuerdo y en segundo lugar la realidad del museo guggenheim bilbao tras una fructífera trayectoria de veinte años

partimos de una realidad completamente diferente a la que teníamos en mil novecientos noventa y cuatro tres años antes de su inauguración la experiencia adquirida y la capacidad de gestión

hacen que nuestra posición sea considerablemente más favorable que la inicial en todo caso

firmado en mil novecientos noventa y cuatro han ido modificándose en la práctica de modo que en la actualidad son muchos los aspectos que se gestionan desde bilbao de hecho

o en colaboración con otras instituciones museísticas internacionales de reconocido prestigio como el moma el metropolitan

en consecuencia esa mayor autonomía práctica del museo guggenheim de bilbao basada en la experiencia adquirida y en la capacidad de gestión demostrada tendrá su reflejo en la renovación del acuerdo

la renegociación se plantea desde una perspectiva de cooperación y colaboración donde ambas instituciones suman un conjunto diverso y plural formando un modelo más enriquecedor

que yo suscribo dijo las que dijo estas que acabo de leer

nosotros solo pagamos falso rotundamente falso

que nos convenía perfectamente analizado y planificado en un ámbito de recuperación de bilbao junto con otras muchas actuaciones acordamos lo que nos interesaba

a algunos agoreros que no se rinden en su esfuerzo por romper un amplísimo consenso social

porque desmienten lo de que solo pagamos estos datos son de dos mil diez

porque vienen a cuento por lo que se ocultó en brasilia por el viceconsejero señor rivera

en sus doce años de vida ha recibido doce millónes de visitantes un quince por ciento de ellos residentes en euskadi

y ciento cuarenta miembros corporativos que soportan el veinticinco por ciento del presupuesto de su actividad algo sin parangón en nuestro entorno el museo ha expuesto más de mil doscientos obras de la reconocida colección permanente

las obras de arte adquiridas para la colección propia durante estos años han duplicado su valor según la evaluación y un tercio de la misma es de artistas vascos el gasto directo realizado en euskadi

nuestras haciendas han recaudado vía impuestos trescientos cuarenta y tres millónes el museo coopera con el mantenimiento de cuatro mil trescientos empleos año

costarían cincuenta millónes de euros más de doscientos periodistas internacionales han publicado crónicas específicas sobre el guggenheim bilbao y han visitado el museo más de dos mil personalidades internacionalmente reconocidas

la cultura la investigación el deporte la actividad económica y la política

en cuanto al funcionamiento también ya he dicho todas las mejoras que

la sailburu paradójicamente cuando ha ocurrido y está ocurriendo todo esto

lo descalifican con más prejuicios que argumentos las instituciones vascas tienen muy claro que el acuerdo a firmar en diciembre se debe plantear desde una perspectiva de cooperación y colaboración atendiendo a las consideraciones y recomendaciones del dictamen de la ponencia

lo van a hacer igualmente aunque no se hubiera aprobado la moción de hoy que es repetitiva y que no aporta absolutamente nada nuevo por cierto visto su aviso amenaza navegantes señor reyes le pido por favor

pues no va a ser el trámite tan breve ya lo siento vamos a ver

no me atrevo a recomendarle un diccionario que es un clásico que es el diccionario de la real academia española digo por lo de la negociación porque estando en política estoy seguro de que usted

en una negociación se sientan dos partes y la cuestión no es cómo se hace que tiene un método sino

de los que se sientan y en esta negociación de la que estamos hablando hoy hay una parte y usted hoy como no es capaz de defender esa postura está mostrando

en fin que yo apuntaba antes hay una parte débil que está en una posición subordinada psicológicamente cuando se sienta que son las administraciones vascas gobernadas por el partido nacionalista vasco es lo que está ocurriendo

y en otra parte hay un señor que sabe muy bien lo que hace el señor usted puede reírse puede decir lo que le da la gana pero está claro que aquí nadie del pnv

a un mes escaso de la firma de ese acuerdo es capaz de decir sí

algo de tal forma que se fortalezca la posición de euskadi vamos a lograr decidir sobre algo porque ha dicho usted que es falso que

pues dígame usted coja el acuerdo que yo me lo he leído entero yo he leído trozos del acuerdo

por las instituciones vascas que siguen pagando cada año dígame usted lo que paga la fundación solomón dónde está el dinero

en los de la fundación neoyorquina o en los de la diputación y el gobierno vasco

hombre es que está además

lo indefendible cuando se está defendiendo de algo que en teoría no ha ocurrido está perdiendo la posición

no van a poder hacer lo que dice la ponencia fíjense su postura está clarísima en la enmienda de totalidad que el doce de junio del dos mil trece

en este parlamento con una enmienda el parlamento vasco considera de gran valor las aportaciones realizadas por los comparecientes estamos hablando de la ponencia en dos mil trece la ponencia

y usted no habla de las resoluciones de la ponencia de que tengan valor

como si han dicho cosas que luego podemos coger algo de aquí algo de allí pero no habla de que una comisión parlamentaria

a favor de eso usted no habla habla de los comparecientes y luego dice e insta al gobierno vasco a que concrete las consideraciones y recomendaciones

por dichos comparecientes es decir que la ponencia

y luego ahora un año después tenía que venir usted a decir que el gobierno vasco va a tener que concretar las consideraciones realizadas por dichos

pero estaba aprobada y luego dice interpretándolas

en una propuesta de negociación es decir viene un compareciente a una ponencia la ponencia escucha al compareciente resuelve vota sale un dictamen viene aquí al pleno se vota sale un dictamen y usted un año después dice no no

para ir a una negociación con eso se ve clara la postura que han seguido hasta ahora

muy en serio el guggenheim es importante para bilbao yo estoy orgulloso del guggenheim de bilbao cuando paseo caminando al lado estoy encantado

de bilbao pero el que una cosa sea buena o que a uno le satisfaga

administraciones públicas como una franquicia que pagamos todos para que decidan otros fuera de aquí y

siendo un árbol que no deja crecer la hierba debajon porque tiene unas exposiciones que vienen decididas por new york pero el arte vasco está desaparecido

el arte vasco del guggenheim y es fácil de entender y a veces en política vale más decir estamos haciendo lo que podemos creemos que eso es importante y lo defendemos que poner la venda antes de la herida de esta manera

que hay una ponencia de este parlamento aprobada y ustedes la van a llevar a muerte la negociación sí o no pues no

hablando de negociación a mí por curiosidad me gustaría estar en alguna negociación entre el señor reyes y el señor arieta

los debates suelen ser interesantes saltan las chispas pero bueno yo creo que lo fundamental

parlamentaria de dos mil doce fue un ejemplo de positividad

de la parte vasca y en favor de lo que tenía que ser el acuerdo es decir las consideraciones de la ponencia solamente voy a leer un punto es sobre el éxito económico urbanístico y turístico del museo guggenheim bilbao y la necesaria ampliación

la cuestión artística y la parte vasca eso es lo que estábamos diciendo y eso es lo bueno yo creo que lo que estamos es

la moción o la proposición no de ley que aprobamos el año pasado esta moción si es que lo que hace es reforzar la parte vasca

yo lo que espero es que eso sea así no enterarme yo luego por los periódicos de noticias de retroceso o de que no se han conseguido cosas la señora uriarte y lo tengo que reconocer

desde el principio a las cuestiones a las recomendaciones a las consideraciones de la ponencia por eso nosotros sí que confiamos en ella por eso además nosotros le damos desde el parlamento

para que ponga sobre la mesa esas consideraciones y esas recomendaciones que nos van a fortalecer a todos vuelvo a decir partiendo del reconocimiento del éxito

le da a la señora uriarte un argumento el parlamento vasco

el parlamento vasco me exige esto y lo tengo que conseguir lo quiero conseguir

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

dos constataciones señor reyes una por muchos datos que le dé

y no va a aceptar nunca porque como han hecho leiv motiv solo pagamos

por lo tanto es igual diga lo que le diga segunda constatación y esta me alegro

que me ha hecho del significado de la palabra negociación

por lo menos no ha venido a decir que negociar es imponer una parte todos sus planteamientos

supongo que es porque realmente cree que no tiene que ser así

dicho esto creo que la posición del gobierno ya la aclaró la señora consejera el otro día esta moción es absolutamente innecesaria después de aquello pero sí que quiero dejar claras un par de cosas cuando me dice lo del señor rivera no es que usted

porque hay una idea esencial con la que quiero terminar esto decía en brasilia no es mía sino que constituye la pieza fundamental del análisis que sobre el llamado efecto guggenheim realizó el periodista bilbaíno

este señala la importancia del consenso político y social como requisito imprescindible para que el efecto positivo

en el fondo es como el cuento del rey desnudo todo lo que rodea el museo destila demasiados elementos cuestionables desde su origen hasta la fecha

por eso este tipo de operaciones crean consenso social y político

social y político y aquí viene el tema cuando este se debilita quién lo debilita quién empieza a hacerlo reaparece aquella vieja pregunta de cómo nos pudimos gastar

estaba en el paro y cuando nos contestamos que al fin y al cabo aquella decisión arriesgada

sin consenso social y político fíjese que contradicción más brutal reaparece la pregunta de si eso lo debimos y lo debemos hacer

hoy en bilbao en euskadi el consenso social y político sobre el museo guggenheim bilbao sigue existiendo

pero aquella fe que le dio origen soporta en que nadie

en que nadie sea medianamente crítico con lo que tiene entre manos sed crítico cuando todo va mal es obligado claro

lo que salió una es lo que nos mantiene pero curiosamente luego en ese mismo discurso como no le quedaba más remedio que dar algún dato positivo

dice el museo constituye la guinda del pastel de una operación compleja

deprimida en los años ochenta por una profunda reconversión de su industria

de ciudades internacionales como en la oportunidad de encarar su fase histórica

esto es un acto de fe o es un acto de previsión y planificación la realidad es que la eficacia completa

de esa nueva fórmula de gestionar museos ha resultado exitosa a pesar de que él mantenía lo contrario por completo en bilbao

y sentido que lo inspiraron pero bueno en qué quedamos acto de fe o razón y sentido las dos cosas

dice bilbao tenía el deseo de un estímulo cultural para la economía local y regional así como los recursos para financiar la operación

experiencia en programación y necesidad de ampliar su mercado de ventas exposiciones y explotación

las necesidades y recursos de las dos entidades ciudad y fundación se complementaban a la perfección y una idea quedaba clara desde el principio par las dos partes

pero la economía era el objeto al cabo de los años la economía ha quedado más que satisfecha y nadie podrá dudar de que el producto ha sido cultural de alta cultura de masas eso sí

entonces aclarando y recapitulando como se dice coloquialmente se juntaron el hambre y las ganas de comer esta es la realidad

en una posición subordinada aquí cada uno tenía una parte cada uno sabía lo que quería y cada uno apostó por algo

quienes dijeron que esto iba a ser un desastre se equivocaron pero algunos encima como suelen decir nada pues usted señor reyes

utilizar literalmente lo que decía el señor rivera pues bueno precisamente por eso ha traído hoy aquí esto sin ninguna necesidad con respecto

ya le dijo la sailburu lo que iba a hacer hombre espero insisto en que no cambie ahora y diga que negociar es sacar una parte todo

si no dice eso probablemente estemos de acuerdo eskerrik asko eskerrik asko